así como toda manifestación de violencia contra las mujeres o de discriminación sexual

violencia sexista es la expresión más grave de las desigualdades

derivadas de relaciones de poder y de sometimiento de las mujeres eusko legebiltzarrak

hiru hilabeterako por acumulación de tareas eta zer egiten zaio

el grupo parlamentario socialistas vascos estuvimos de acuerdo con la

un año aproximadamente en el cual se presentaba una iniciativa también de impulso al gobierno para que mejorara la calidad

ofertas públicas que mejorara la calidad de las relaciones con los sindicatos para que afinara los análisis de vacantes y se afloraran todos

la posibilidad de ofertarlos en ope y estuvimos de acuerdo entonces y estamos de acuerdo ahora con la nueva iniciativa

vuelve a ser de impulso al gobierno para que realmente se dé cuenta de que

los servicios sanitarios a la población son los trabajadores los trabajadores nuestro objetivo

en sí la calidad de las relaciones laborales ni de que los representantes sindicales tengan de verdad opción a hablar con el gobierno nuestro objetivo es

la mejor posible sea la mejor posible naturalmente con las estructuras funcionales y económicas que nos permite la situación actual

afinar las relaciones con los sindicatos

de negociación y que no sean solo una presentación por parte del gobierno de una oferta y se acabó lo tomas o la dejas y luego intentar la división sindical mediante negociaciones bilaterales no puede ser eso

compartir con los sindicatos las tareas de decisión de planificación y llegar a acuerdos hasta donde se pueda mire empezamos la legislatura

petición por parte de una comisión de eventuales siempre que se genera una comisión es porque el colectivo siente que tiene problemas y que desea resolverlos

sobre la disminución de contratos que estaba habiendo en el grupo de eventuales que venían trabajando habitualmente y que estaban en aquel momento abocados al paro eran un porcentaje importante de eventuales era una comisión importante de eventuales por qué motivo pues porque no se sustituía tanto como antes

no se sustituía tampoco vacaciones ni ausencias para hacer cursos ni bajas ni por supuesto se sustituían las jubilaciones incapacidades y fallecimientos

los eventuales habrán seguido sufriendo toda la legislatura esta crisis

mientras que los sindicatos habrán seguido peleando para mejorar las condiciones laborales sin conseguirlo pero evidentemente la pérdida más importante es la de los eventuales

y qué es lo que piden tanto los eventuales como los sindicatos como este parlamento pues que se hagan unas ope más suficientes en número de oferta de plazas vacantes antes el gobierno tenía un motivo legal

que limitaba creo que al veinte por ciento esa restricción ha desaparecido

en el departamento rápidamente una respuesta

ofertar más plazas yo quisiera ver esa voluntad en el gobierno

a anunciar que efectivamente se pone a la cabeza de las comunidades autónomas a la hora de aprovechar la eliminación de la restricción de las tasas

porque es la consecuencia lógica de la voluntad manifestada por usted a lo largo de toda la legislatura y que se puedan ofrecer como digo

o jubilación pero además lo que le he dicho antes que afinen los procedimientos para analizar las plazas eventuales

tiene un porcentaje importante de plazas eventuales que no tienen plaza estructural no tienen número de plaza pero que son necesarias para la prestación del servicio y que se cumpla en aquel

analizar las plazas que llevan más de tres años como eventuales para transformarlas en estructurales y que esas

de tareas porque son en realidad acumular dos plazas en una esa también es otra vacante que hay que ofertar creemos que tienen la posibilidad de hacerlo quisiéramos ver al consejero da ese paso y que nos anuncia que efectivamente

y que nos escuche porque aquí hay un incumplimiento de lo que acordamos hace un año

voluntad tiene política de aceptar lo que se apruebe hoy pero lo que sí le voy a decir es que nosotros no nos vamos a cansar de reivindicar aquello que consideramos correcto

en el nivel de calidad de servicios que tiene hoy porque la responsabilidad del consejero no es la gestión del día a día es la planificación del futuro
y ahí le queremos ver nada más y muchas gracias eskerrik asko roncal andrea

gracias señora presidenta seré breve este debate

que hoy nos plantea bildu ya lo tuvimos hace unos meses en relación con los planteamientos que finalmente se aprobaron en la enmienda de transacción que aprobaron los votos del partido socialista y de bildu nosotros

en una actitud sindical y entrando a detalles y actitudes que correspondían al propio gobierno vasco

en realizar ofertas públicas de empleo políticas de empleo públicas adecuadas y necesarias y también a los sindicatos en un papel que debía ser realista que debía ser objetivo y constructivo y en esas mismas claves nos afirmamos hoy es el gobierno el que tiene que

y sus necesidades de puestos de trabajo y de empleo público nuestra función tiene que ser ver que el gobierno hace las cosas o no no decir cómo tiene que hacerlas en ese aspecto tan administrativo y tan concreto osakidetza es el buque insignia de la administración vasca podríamos decir

gestionarlo con mucha responsabilidad y mucha mano firme y con respuesta a esas constantes necesidades efectivamente el diálogo y la transparencia están ahí

debemos instar a que se produzca y sobre todo hacerlo con la ley en la mano hacerlo con la ley en la mano en todos

ocurrentes estamos hablando del acceso al empleo público y de las garantías para los ciudadanos y eso se hace cumpliendo las normas que tenemos y

responsabilidad presupuestaria responsabilidad organizativa responsabilidad administrativa

el desmantelamiento de la sanidad pública vasca es un discurso siempre

hay que mirar los puntos fuertes y entender que los hay y

centrales sindicales y de quienes participan y deben participar de una manera más

este proceso en aquel debate de hace unos meses mi grupo ya consideraba que el tema es efectivamente tema de fondo

lo que tenemos que definir como esa política de empleo público relacionada con la calidad

desde luego de los trabajadores y de las trabajadoras esta cuestión tiene que ser definitivamente abordada por el gobierno y por los agentes sociales entendemos que el papel del parlamento

instar a que eso se produzca y conocer eso sí el proceso ese proceso negociador analizarlo y las consecuencias del mismo ese debe ser nuestro papel nuestro punto de vista

enmienda que votaremos a favor luego

desde luego cambia y evoluciona y esa definición de cambio

detectando necesidades y posibilidades de actuación y también también los agentes sociales también los sindicatos trasladando propuestas y reivindicaciones responsables y realistas que busquen de verdad garantizar la calidad del servicio vuelvo a decir

en definitiva para analizar la cuestión nosotros entendemos que nuestro planteamiento si es ofertar plazas

profundizar desde luego en procesos transparentes abiertos de ofertas públicas de empleo en todos los ámbitos no solamente en osakidetza pero sin

la normativa vigente porque en planteamientos que se hacen en propuestas como estas hay cuestiones que se escapan desde luego del cumplimiento de las leyes y eso no puede ser en materias tan administrativas tan organizativas tan presupuestarias

básica de normativa general o de normativa nuestra autonómica nosotros somos el parlamento vasco señora ubera y señora roncal nosotros no somos una

en aquel debate y desde luego viendo la enmienda de transacción

de diálogo de encuentros o desencuentros están quienes están gobierno centrales sindicales pues yo echo de menos que en una enmienda de transacción

no haya también una instancia a la actitud proactiva a la actitud responsable a la actitud constructiva o positiva

también ellos pueden ser analizados en relación con muchas circunstancias no lo vamos a hacer nosotros en una proposición no de ley de estas característica pero en cualquier caso falta desde luego

de sus mesas de negociación y del papel de unos y otros falta desde luego que ustedes también puedan hacer una introspección incluso una autocrítica en relación con su función de parlamentarios sindicalistas en estas cuestiones bien nosotros hemos presentado una enmienda de totalidad ya lo habíamos hecho

instar al gobierno vasco a garantizar el sistema y reforzar el sistema vasco de salud y no ver

lo vamos consiguiendo con este gobierno con los anteriores los de hace

las líneas estratégicas pues bueno ahí tenemos que estar a seguir

el sistema vasco de salud que deberá seguir siendo público universal y de calidad

las reuniones de la mesa sectorial en cuanto órgano competente para negociar las condiciones laborales de las personas trabajadoras en osakidetza está claro ahí debe ser el ámbito en el que haya

y sus representantes sindicales para ahí adoptar las medidas

el gobierno desde luego y eso y que los sindicatos también colaboren esa cuestión y desde luego instar a que siga dotando a osakidetza de los recursos humanos y medios económicos necesarios para garantizar a todas las personas el derecho a

ahí tenemos que poner las claves ahí tenemos que poner la distancia

también es garantizar una buena política de empleo público y de relaciones laborales eso es así y por eso nosotros votaremos en contra de la enmienda de la olvidadiza enmienda de transacción y
votaremos a favor de la nuestra muchas gracias eskerrik asko barrio jauna

muchas gracias presidenta buenos días a todas y a todos nosotros compartimos muchos argumentos muchas ideas muchas reivindicaciones que se apuntan y se señalan por los diferentes grupos políticos

tanto en la iniciativa original como en las enmiendas que los distintos grupos han presentado y en concreto también compartimos la iniciativa aprobada por este parlamento el día treinta de octubre de dos mil catorce aunque incumplida por el gobierno vasco sobre esto también creo que habrá que hablar en algún momento sobre las iniciativas que se aprueban en este parlamento que no sirven absolutamente para nada porque el gobierno vasco

por encima del bien y del mal y nada le afecta pues sigue en su camino de hacer oídos sordos a todo lo que plantea este parlamento yo creo que esto es una cosa muy seria que los distintos grupos que al menos de momento no hacemos la ola al partido nacionalista vasco deberíamos tomar cartas en el asunto multitud de iniciativas parlamentarias que se aprueban en este parlamento y el gobierno vasco del partido nacionalista vasco pasa absolutamente de cumplirlas porque

que está por encima del bien y del mal y que nada le afecta y efectivamente esta es una de esas iniciativas que se aprobó en este parlamento y que el gobierno no atiende digo que compartimos una serie de objetivos al menos con algunos otros grupos parlamentarios de esta cámara

reducir la eventualidad y la precariedad garantizar la calidad de los servicios de nuestro sistema sanitario público

abrir una negociación política con el estado para acordar un número de plazas para la ope también recogido en algunas de las enmiendas de los distintos grupos y en la de upyd

uno de los argumentos también recogidos en la enmienda del grupo socialista garantizar y reforzar el sistema vasco de salud que deberá seguir siendo público universal y de calidad

de euskadi y garantizar a todas las personas el derecho a la protección de la salud y a una atención sanitaria de calidad ofreciendo una cobertura pública universal reducir el porcentaje de contratación temporal y un largo etcétera nosotros hemos presentado una enmienda

en solitario y es que nosotros proponíamos instar

cuya oferta de plazas supere de forma notable las tasas de reposición con el objetivo de rebajar la tasa de temporalidad actualmente existente en el servicio vasco de salud y dar estabilidad a la plantilla la nueva ope planteábamos que se desarrollara en el primer semestre

han preferido firmar otra transaccional cosa que nosotros evidentemente respetamos hace no muchos meses se debatía la propuesta citada por la señora

y con lo que nosotros básicamente estamos de acuerdo al menos con su filosofía ya que upyd siempre ha defendido una sanidad universal pública de calidad y que preste un óptimo servicio

dignas decentes y unos medios disponibles que les permita a estos trabajadores realizar correctamente su trabajo

mejor servicio público prestarán a los ciudadanos nadie puede negar los recortes que se han producido en los últimos años en el ámbito sanitario por mucho que

como ajustes indispensables para mantener los servicios públicos esenciales pero lo cierto es que durante todos estos años se han producido una serie de recortes en el ámbito sanitario que upyd ha venido denunciando por activa y por pasiva en sus diferentes intervenciones

había ido mejorando paulatina y progresivamente durante décadas gracias al esfuerzo de muchos

y los empleados públicos sin embargo esa percepción se ha ido rompiendo en los últimos años y la causa directa y real han sido los recortes impuestos por los gobiernos central

había quien hablaba antes en concreto el señor barrio de la motivación necesaria que deben tener los trabajadores sin embargo hay que recordar que cuando se impulsan recortes la calidad se resiente

o se reducen las sustituciones es posible que determinadas motivaciones se vean reducidas como consecuencia de todos esos recortes y es lo que ha venido ocurriendo y como consecuencia de estos recortes aumenta el estrés y la presión sobre los profesionales

y aumenta la inseguridad cuando se obliga a los profesionales a rotar por distintos servicios porque no los conocen lo suficiente lo que afecta

y aumenta el enfado cuando se suspende la carrera profesional que ya estaba aprobado lo que también repercute

etcétera es un cúmulo de factores que tiene una consecuencia directa

es peor que la que se ofrecía hace unos años es mejor que la que se ofrece en otras comunidades autónomas pero es peor que la que se ofrecía hace algunos

deben detenerse los recortes en el ámbito sanitario para garantizar los mejores servicios sanitarios posibles y recuperar los niveles de ejercicios anteriores y los niveles que se ofertan en algunos de los países de nuestro entorno

oportunas para cubrir las bajas de jubilación fallecimiento creaciones de nuevos puestos en nuevos centros de salud hospitales etcétera y en eso

muy por detrás de las necesidades reales es decir se convocan menos ope de las necesarias y con menos plazas de las necesarias

socialista y eh bildu una transaccional que recoge ciertamente cosas interesantes sin embargo nosotros vamos a votar a favor de la nuestra

instar al gobierno vasco al departamento de salud a negociar con el gobierno de españa las bases de una nueva ope cuya oferta de plazas supere de forma notable las tasas de reposición con el objetivo de rebajar

en el servicio vasco de salud y dar estabilidad a la plantilla es posible creo yo que esta enmienda de upyd podría ser aprobada por este parlamento porque me parece que es perfectamente razonable nosotros no vamos a rechazar la transaccional firmada entre eh bildu y el grupo socialista

apoyarla me voy a abstener y en el caso de que no salga pues pido el voto a todos los grupos para la enmienda de upyd nada más y gracias eskerrik asko maneiro jauna

del departamento a que tal y como han anunciado públicamente apruebe nuevas ope que permitan dotar

y además que lo haga respetando el principio de seguridad jurídica precisamente para evitar problemas y no generar falsas expectativas

que siga con los procesos de cobertura de vacantes ya iniciados al objeto de completar la plantillar estructural y poder reducir

en función del análisis y la evolución de la plantilla que ya se está realizando impulsar procesos de ampliación de plantilla ligados a la apertura y desarrollo de nuevos centros

simplemente una idea señor darpón para que le de una vuelta para que reflexione y a ver si de aquí a un tiempo

y nosotros estaremos dispuestos dispuestas en ese caso para apoyarle la idea es déle una vuelta ampliar el sistema de incorporación

la ope y han quedado sin plaza puedan acceder a plazas vacantes con el objetivo de rebajar la tasa de temporalidad actualmente existente e incrementar y garantizar la estabilidad una idea

eskerrik asko mahaiburu andrea retomo la idea de la señora ubera porque me parece que abre un nuevo camino

el sistema de ingreso mediante ope en la sanidad pública no es un sistema único absoluto y que sea inamovible y que sea general en todos los países y que sea el mejor sistema de incorporación de una selección de personal

de hecho antes no está tan lejos en el tiempo

el concurso abierto y permanente por el cual entraban exclusivamente por méritos

personal de enfermería y auxiliares de enfermería nunca generó problemas al contrario

muy ágil de incorporación y estabilización de la plantilla y de ocupación inmediatamente de las vacantes yo no digo que haya que volver a un sistema de ingreso por méritos

efectivamente pues quizá se puede analizar un sistema

mixto como el que ha planteado la señora ubera y que se puede matizar y mejorar

aprobación de unos mínimos de hecho ya garantizados por la titulación académica y una serie de méritos para poder ocupar plazas de un modo mucho más ágil que las ope que cuestan mucho dinero mucho esfuerzo

anualmente creo que la periodicidad mejor sería bianual pero entre tanto se pueden generar muchas vacantes y desde luego creo que merece la tema analizar ese tema

hay que planificar el futuro y hay que mejorar si es posible los procedimientos como digo de dar fijeza a la plantilla no sé si se podía esto generalizar a todos los funcionarios

no es administración pública como tal es un ente público de derecho privado que tiene

tanto de gestión de los recursos materiales como de los recursos humanos y por poner otro ejemplo que

miren hay incumplimientos he dicho

de incumplimientos mire sin ir más lejos las ofertas que se hacen actualmente son realmente en algunas especialidades francamente bochornosas

el de las plazas de rehabilitadores mire en las propuestas de resolución que hicimos en las aportaciones al plan de salud

del desarrollo de los servicios de rehabilitación de osakidetza no hemos visto

pasos para desarrollar unos servicios que creemos que tienen francamente posibilidades de mejora y volvemos a lo mismo nuestra preocupación

ante la población de una manera satisfactoria como marcan las encuestas de satisfacción sino en mejorar todos los procedimientos para continuar con un nivel

y de satisfacción de la población de una manera semejante o mejor si fuera posible

nosotros echamos en falta que haya un llamamiento también integral en esta

y que se haga también a los sindicatos no a un análisis constructivo y realista de todo

la señora roncal hablaba de que mejorarán las condiciones con los sindicatos sí

la enmienda de transacción tiene dos partes le falta una está bien claro la parte de instar al gobierno de españa

siempre de algunos discursos a que respete el autogobierno el gobierno de españa lo hace escrupulosamente o sea que es innecesario ese

pero en cualquier caso se aprueba la enmienda de transacción para hacer lo de siempre no luego insta al gobierno vasco efectivamente hay una serie de cuestiones a las que se insta en relación con la negociación

de negociación la mesa sectorial a la información sobre las plantillas a las plazas eventuales pero falta la tercera instancia es decir los sindicatos presentes en la mesa de negociación de osakidetza también tendrían que recibir

enmienda de transacción o va a recibir el gobierno vasco una certificación de este parlamento del parlamento vasco

en las mismas claves que pone en el punto número dos de la instancia al gobierno vasco a garantizar que la mesa sectorial tenga un verdadero carácter de negociación colectiva

porque ellos también pueden contribuir a esa cuestión o sea que esta esta enmienda de transacción está absolutamente incompleta y mientras ustedes solamente lo vean desde el punto de vista sindical

y nosotros lo hacemos así muchas gracias eskerrik asko barrio jauna maneiro

eta hau ez dut nik esaten federación de asociaciones para la defensa de salud

eta esaten dute besteak beste osakidetza que no ha entrado

que ha mantenido la sanidad universal y que la percepción de los ciudadanos de tener un sistema sanitario bueno es generalizada

la ope anterior de la legislatura anterior precisamente cuando ha sido

donde mayor índice de suspensos ha existido dónde queda entonces la valoración de los méritos orduan

más de dos meses desde que nuestro grupo presentó esta proposición de ley al parlamento

porque sigue pendiente a día de hoy el anuncio del gobierno del señor rajoy de impugnar ante el tribunal constitucional dos leyes aprobadas por este parlamento la ley de vivienda y la ley de medidas adicionales de protección medioambiental para la extracción de hidrocarburos no convencionales mediante fractura hidráulica el fracking y aunque el contencioso está ahora en fase de negociación

para abordar estos conflictos antes de remitirlos al tribunal constitucional no hay que descartar que el señor rajoy como último acto de despidida de la moncloa lleve adelante

porque lamentablemente no es desde luego la primera vez que el actual gobierno central cuestiona el ejercicio de competencias que corresponden a nuestra comunidad autónoma

utilizara el autogobierno para paliar el recorte del derecho fundamental a la sanidad universal que aplicó el partido popular

ni conflictos de competencias ni recursos cruzados en la mayoría de las ocasiones debido a ese enfermizo afán de recentralización manifestado por el gobierno del señor rajoy

y necesario el pronunciamiento que solicitamos de esta cámara con el ánimo de que pueda recabar

de los grupos parlamentarios por un lado recabar del gobierno vasco mayor energía y diligencia

en materia de vivienda suelo urbanismo y medio ambiente en todas aquellas instituciones donde sean cuestionadas y esta petición no es ni mucho menos gratuita

que las dos normas sobre las que pende la impugnación del gobierno del pp fueron aprobadas por mayoría de este parlamento pero ninguna de las dos fueron impulsadas por el gobierno vasco

el pnv la ley que establece el derecho subjetivo de todos los vascos y vascas a una vivienda digna es consecuencia de una iniciativa de este grupo de los socialistas vascos

y la norma que opone el fracking medidas adicionales de protección ambiental es fruto de una iniciativa legislativa popular

y recuerdo esto porque las primeras reacciones de miembros del gobierno vasco a la aprobación de ambas leyes y al anuncio del gobierno central sobre su impugnación fueron bastante

o del consejero de empleo señor toña que parecían desprender más que voluntad de defenderlas una cierta complacencia ante la posibilidad de que las impugnaciones del gobierno del pp

que no les gustan demasiado tengo que reconocer que con posterioridad y por insistencia de este grupo el gobierno de euskadi abandonó actitudes reticentes

pronunció aquí el pasado viernes anticipando la línea que el gobierno va a mantener en la comisión bilateral o donde sea en defensa de las competencias de la comunidad autónoma lo que defendemos dijo es que euskadi tiene pleno derecho

y que intentar coartar la capacidad de legislar es una injerencia del gobierno de españa que atenta contra el autogobierno vasco nos alegramos de que esto se haya dicho así y que vaya a ser así

como máximo órgano de representación del país vasco y como la cámara que aprobó estas dos leyes inste de forma expresa al gobierno para que las defienda con todos los medios legales

solicitar al gobierno que preside el señor rajoy que respete al máximo al autogobierno de euskadi y cese en el cuestionamiento sistemático

atribuye a la comunidad autónoma creemos que el contenido de nuestra proposición

de esta cámara de hecho la formulación de la enmienda a la totalidad presentada por eh bildu es en su texto original muy similar y no habría habido

con el partido nacionalista vasco en una especie de travestismo donde los que eran más soberanistas se vuelven estatutistas y los que eran estatutistas se nos hacen soberanistas de repente

tanto por su enunciado como por su tono y espero de verdad que solo responda aunque creo que la realidad me va a desengañar a que el señor egibar tuvo un mal día y se dejó llevar por sus instintos

que es la defensa jurídica de dos leyes concretas que ni siquiera cita en su enmienda por cierto ni a la de transacción tampoco por el contrario se adentra en otra discusión que puede tener conexión con el asunto pero lo hace fuera de lugar

pretendiendo arrancar un pronunciamiento de este parlamento que dé respaldo por la puerta de atrás a un planteamiento particular de su partido un planteamiento

como es la ponencia de autogobierno esa a la que ustedes ponen en valor tan a menudo y que tan a menudo también desvirtúan

sin embargo usted con esta enmienda se desmarca clamorosamente por cierto de la línea establecida por el lehendakari urkullu vuelve a declarar muerto el estatuto como en los tiempos de lizarra

resucita nuevamente el plan ibarretxe y como digo de matute pretende que este pleno respalde a ciegas y de forma extemporánea una posición que es suya de su partido legítima pero suya solamente una posición la del nuevo estatus político

ni debatida todavía en este parlamento ni por supuesto en la ponencia de autogobierno y me gustaría saber cómo encaja lo que se declara en la enmienda del pnv

del pasado veinticuatro de septiembre salvo que uno de los dos o los dos

y de aspirar a esa todavía nebulosa nueva fórmula de relación que se propone

ha abierto la puerta a la institucionalización de euskadi su ejercicio nos ha permitido alcanzar las cotas de bienestar calidad de vida y confianza institucional más elevadas

de una cosa muy concreta de defender el autogobierno de la ciudadanía

y a la calidad de los servicios que recibe la sociedad vasca el que asegura a todos la sanidad la educación la protección social la vivienda un medio ambiente sano etcétera etcétera de eso habla esta propuesta de lo otro ya tendremos tiempo de discutir señor egibar cuando toque

entre quienes lo tienen todo y los que apenas tienen nada el que garantiza la igualdad de oportunidades que no da la cuna de eso hablamos en esta iniciativa que yo espero aunque la verdad con bastante desconfianza en este momento que tenga el mayor respaldo de esta cámara

y del fracking si llega a formalizarse sea el último ataque contra el autogobierno de euskadi que se realiza desde el gobierno de rajoy y lo sea porque

energía no es una petición gratuita son leyes que no han sido del agrado del gobierno vasco actitudes ambiguas tibias del consejero erkoreka de toña

creo que el gobierno vasco desde el primero momento desde que se aprobaron las dos leyes

de este gobierno lehenengo momentutik tan es así que la última referencia la pregunta

el viernes pasado con respecto a la ley de vivienda yo creo que satisfizo diría que cuasi plenamente

expuso aquí en lo que puede ser la defensa de la posición

una perspectiva estrictamente de legalidad dice usted que la enmienda que presenta el partido nacionalista vasco no tiene nada que ver

con lo que usted propone yo creo que sí porque aparte de instar al gobierno vasco para que los servicios

en la defensa de los intereses sí habla de un tema troncal del autogobierno en su enmienda cuando dice

y a renunciar al cuestionamiento sistemático del autogobierno de euskadi cuestionamiento sistemático

de los treinta y seis años y a la hora de calificar el estatuto dice fruto de un acuerdo entre sensibilidades políticas diferentes que ha hecho posible

que presenta el partido nacionalista vasco y en este momento es parte también de la transacción habla precisamente de la desaparición de ese consenso

y le otorgó esa caracterización política ese consenso hace muchos años que desapareció y las consecuencias negativas

ese es el planteamiento lo que está ocurriendo aquí y también ha salido de rondón el tema del concierto económico es que a las instituciones vascas y a lo que es el estatuto de autonomía siempre se le somete a un juego a un juego primero

de cuestionamiento de acusaciones de privilegios etcétera etcétera y después a la vez renegociar o sea hay un cuestionamiento permanente que te obliga nuevamente a renegociar y en el mejor de los escenarios obtener una neutralidad

o te cuestiona y eso es lo que está haciendo el partido socialista obrero español con el tema del concierto económico

se saca de vez en cuando a pasear a unos cuantos ministros en este caso también o ex ministros que hablan del tema el partido popular se apunta al juego entonces hay un cuestionamiento estructural

para que los vascos seamos conscientes de lo que tenemos y que está en peligro olvidémonos de otras aspiraciones

y tiene que ver con el día a día como corre peligro aferrémonos a esa posición de defensa del concierto económico eso es lo que se está buscando

diciendo fíjese los vascos lo que tienen y a ver si pueden salvar el concierto económico cuestión que ustedes no van a tener ni de lejos

sí es pertinente decir qué es lo que pensamos del estatuto de autonomía defendido por el partido nacionalista vasco y por las instituciones vascas

desde el veinticinco de octubre del setenta y nueve señor pastor

en el incumplimiento del estatuto de autonomía los distintos gobiernos presididos por el partido socialista obrero español

la seguridad social o incluso de la transitoria quinta cómo se puede llamar a una

transitoria que pensaban los negociadores que se iba a articular el acuerdo en seis meses ocho meses a lo más un año y lleva treinta y seis años

de transferencias que tenía que haber resuelto el cumplimiento del estatuto de autonomía del primer año hombre creo que tenemos derecho a hablar de esta materia con absoluta legitimidad pero no queremos confundir a la ciudadanía que no se nos distraiga ahora con el cuestionamiento del concierto económico para que este pueblo

o desplace en el tiempo reivindicaciones legítimas también de este parlamento porque nosotros sí respetamos y defendemos

este parlamento vasco pueda aprobar todas incluidas las que tienen referencia o que ver con la estructura del país

que es de lo que la ponencia de autogobierno también va a tener que hablar

y tenemos perfecto derecho a introducir el segundo y el tercer punto en la medida en que han sido pronunciamientos de esta cámara el treinta de diciembre

mayoritariamente y volverá a hacerlo cuando proceda

que el partido nacionalista vasco atiende y respeta amaitzeko nik aurreko baten esaten nuen

sí muchas gracias presidenta nos encontramos ante una nueva iniciativa parlamentaria para no tanto defender el contenido de dos leyes aprobadas por este parlamento la ley de vivienda y la ley del fracking como para defender las competencias propias

con esos mimbres el debate se ha convertido efectivamente como estamos viendo en un debate sobre el autogobierno pero creo que a la vista de la iniciativa parlamentaria del grupo socialista era previsible que esto fuera

de ahí las enmiendas que han presentado los distintos grupos y de ahí la transaccional que finalmente han firmado el grupo nacionalista

la iniciativa era un nuevo intento del grupo socialista de ocupar cierto espacio nacionalista y para seguir defendiendo esa falsa máxima nacionalista que reza que cuanto más autogobierno mejor incluso independientemente de lo que se decida hacer

y esas competencias podemos concluir por lo tanto que la iniciativa del grupo socialista no ha tenido éxito el partido nacionalista vasco y eh bildu han ido más allá el nacionalismo siempre va más allá el nacionalismo ofrece nacionalismo y el problema es que el partido socialista ofrece nacionalismo aunque sea nacionalismo en menú infantil analicemos

critica inicialmente que el gobierno de españa haya anunciado la intención de impugnar las leyes de vivienda y de fracking y recuerda que el gobierno vasco de patxi lópez respondió con contundencia cuando hechos semejantes

los socialistas vienen a decir al partido nacionalista vasco tomen ejemplo de lo que nosotros hicimos

y que estos sean contundentes esa es la mejor forma de responder contundentemente por lo demás el grupo socialista recuerda que lakua ha impulsado varios recursos de inconstitucionalidad y conflictos positivos de competencias

impugnaciones sistemáticas del ejecutivo de españa el grupo socialista dejaba claro que está dispuesto a acompañar al gobierno vasco en la defensa de las supuestas competencias

que tanto el gobierno vasco como el gobierno de españa están en su perfecto derecho de recurrir e impugnar todas las normas que consideren y que deberá ser el tribunal constitucional

en cada caso o la comisión bilateral antes también en estos casos concretos de la ley de vivienda que apoyamos y la ley de fracking que no apoyamos

constitucionales y aprobadas según las competencias que nos corresponden en todo caso aceptaremos lo que diga el tribunal constitucional o la comisión bilateral

buscando quizás la contradicción en el pnv para que tenga que defender su gobierno incluso una ley que no comparte la ley de vivienda en todo caso

por qué derroteros está yendo el debate y las enmiendas presentadas si analizamos

que no se atrevió a presentar en otros debates habidos en esta cámara sobre autogobierno o modelo de estado y nosotros lo agradecemos el grupo socialista presenta una iniciativa sobre el autogobierno y el partido nacionalista vasco acepta el debate a mí esto me parece en principio bien

qué es lo que dice esta enmienda del partido nacionalista vasco en el primer punto lamenta los incumplimientos reiterados del estatuto de gernika pero olvidando

y no pueden ser traspasadas automáticamente y esto conviene recordarlo tantas veces como sea necesario

en el estatuto debe haber una negociación entre el gobierno vasco y el gobierno de españa por otro lado que el estatuto no esté completado completamente

desde luego no implica que todos los grupos debamos exigir al gobierno vasco que exija todas las competencias pendientes a veces es mejor que determinadas competencias en un lugar superior y por lo tanto que el gobierno vasco no las asuma por eso es habitual que upyd no suela instar al gobierno vasco o al gobierno de españa a traspasar determinadas competencias porque consideramos que eso no es bueno para el conjunto del país y por lo tanto para el conjunto de la ciudadanía

vuelve a reivindicar la idea según la cual un estatuto autonómico puede modificar

olvidando nuevamente que la reforma de la constitución española la decidimos todos los ciudadanos españoles que el modelo territorial del estado lo decidimos todos los españoles y que el derecho a decidir sobre cuestiones que nos afectan a todos corresponde al conjunto de los ciudadanos y vuelven a resucitar efectivamente el plan ibarretxe que tanta división y tanto enfrentamiento provocó en euskadi en su tercer punto

como si euskadi no formara parte de españa del modo tramposo habitual que el nacionalismo vasco lleva manipulando las palabras y contando mentiras o medias verdades

o no y trata de vendernos otra mentira que el derecho a decidir nos asiste y que los ciudadanos vascos no compartimos ciudadanía con el resto españoles y de la transaccional que finalmente ha firmado valen los mismos argumentos porque prácticamente se recogen esas mismasideas

el derecho a decidir que vuelven a reivindicar aquí hoy el grupo nacionalistas vascos y eh bildu no existe ese derecho a decidir el derecho a decidir sobre los asuntos que

corresponde al conjunto de los ciudadanos españoles y aquí podremos tomar decisiones en virtud de nuestras competencias pero no existe ese derecho a decidir que vuelven a reivindicar

y eh bildu que vuelve a reivindicar el nacionalismo es falso ese derecho a decidir que ustedes plantean no existe por lo tanto ante tantas mentiras

urgentemente dos cosas primera pedirle al lehendakari el libro que le regalé el jueves pasado

efectivamente usted también lo necesita y segunda cosa que tiene que hacer escucharme atentamente la constitución española

pero a través de los procedimientos legales establecidos la constitución española debe reformarse sí pero con la participación y el derecho a decidir de todos los ciudadanos españoles y la constitución española debe reformarse sí pero no para fraccionar más el país sino para fortalecer la unidad del mismo y defender más bienestar

resulta que en euskadi decir que alguien defiende una euskadi unida y fuerte es algo

y sin embargo cuando eso mismo se dice en relación al país del que formamos parte es decir españa resulta que es cosa de fachas si uno dice que necesitamos una euskadi unida y fuerte

y sin embargo cuando alguien dice que queremos una españa unida y fuerte es cosa de fachas si vuelve a decirse lo mismo en relación a europa

si alguien dice que queremos una europa unida y fuerte

yo reivindico las tres ideas una euskadi unida y fuerte una españa unida y fuerte y una europa unida y fuerte

o tratarán de aprovecharse de la debilidad del estado tal como le dije al lehendakari en el pleno de política general para seguir dando pasos

no tanto lo que ustedes hagan sino lo que hagamos el resto y no solamente en este parlamento sino en el conjunto de españa porque sin duda el nacionalismo los nacionalismos son un grave problema para españa pero quizá sea todavía un problema mayor

las incoherencias los complejos los miedos de esos partidos políticos no son nacionalistas pero que a la hora de la verdad se comportan como si lo fueran en conclusión y por cerrar el debate de esta iniciativa uno tanto el gobierno

que consideren son inconstitucionales o invaden competencias dos que la comisión bilateral o en su caso el tribunal constitucional dictaminará y en este punto por cierto cabe recordar la politización de la justicia tanto el consejo general del poder judicial como el tribunal constitucional como el tribunal supremo están colonizados por los partidos políticos y urge su descolonización su profesionalización y su despolitización para que sus resoluciones

legitimidad y tercero este debate vuelve a poner de manifiesto que españa necesita una reforma del estado autonómico una reforma

para reformar el modelo autonómico y clarificar delimitar y definir perfectamente las competencias de las que dispone cada gobierno gobierno de españa gobierno

porque si no estos debates volverán tantas veces como en fin haya un conflicto competencial entre el gobierno vasco y el gobierno de españa por lo tanto es urgente ese debate sobre el debate autonómico sobre el estado autonómico para clarificar claramente las competencias y que cada gobierno sepa exactamente qué competencias tiene y cuáles
puede ejercer gracias eskerrik asko maneiro jauna

uno que mantiene todavía algo de ingenuidad de buena fe digamos

acreditado queda venía a este parlamento para debatir

por respeto al proponente el debate en los términos planteado pero también tendremos que entrar en alguna de las manifestaciones algunas consideraciones políticas que se han hecho en esta tribuna

todos podríamos llegar a convenir a acordar que un estado de derecho moderno se sustenta

en la observancia y en el cumplimiento de la ley para su funcionamiento las normas de las que ese estado de derecho se dota

pero también obliga en cuanto a derechos y obligaciones a las propias administraciones públicas y en concreto a los gobiernos les otorgan también por lo tanto derechos a los ciudadanos pero también derechos a las administraciones y a los gobiernos a la hora de defender sus intereses la ley o una supuesta vulneración

en los estados por lo tanto en los estados descentralizados modernos

dota por tanto de herramientas a los gobiernos para defender

cuando entiendan legítimamente equivocada o acertadamente pero legítimamente cuando entiendan que estas competencias que estos derechos han sido

y esto sucede en todos los países descentralizados modernos sucede en alemania fundamentalmente y sucede en cualquier otro país que a ustedes se les ocurra descentralizados

los descentralizados o el estado federal en este caso el alemán y en este caso nuestro el estado central tiene herramientas legales para defender sus derechos sus competencias cuando crea que estas han sido vulneradas

las unidades permítanme utilizar esta expresión descentralizadas tienen los lander en alemania un procedimiento perfectamente establecido para defender

y lo tiene nuestro estado autonómico dotan de herramientas para defender esa vulneración supuesta vulneración de competencias y esto

dentro del normal funcionamiento del sistema de nuestras instituciones

y sobre esta materia ha habido cierta impostura dramática

otras intencionalidades generalmente negativas desde el punto de vista político a la utilización de esas herramientas legales que dotan a las administraciones para defender

derechos o sus competencias pues bien hoy nos encontramos con un debate que rehuye esto a iniciativa del partido socialista

que dice que todo esto es una conspiración poco más o menos que judeo masónica para vaciar de contenido

a esa tesis de victimista del partido nacionalista vasco y del gobierno

habla de invasión competencial hasta ahora solo el partido nacionalista vasco ahora también se suma

cuando ni tan siquiera se han llegado a presentar todavía recursos ante el tribunal constitucional el gobierno central todavía no ha presentado ningún recurso de constitucionalidad desde luego sobre las normas aludidas sobre las leyes aludidas en esta lo que ha hecho el gobierno central por cierto a diferencia del gobierno vasco que sí tiene recurridas ante el tribunal constitucional algunas normas del gobierno central

pero el gobierno central todavía no ha recurrido todavía no ha acudido al tribunal constitucional a recurrir

que el propio proponente lo ha reconocido un instrumento que es previo que es estrictamente político que es esa comisión arbitral es esa

de las instituciones es el normal funcionamiento del estado de derecho

recurre a un tribunal y antes incluso recurre a un órgano político para dirimir las diferencias ya está esto es lo que hay se hacen interpretaciones

se hacen interpretaciones de quien cree que esto es una conspiración es una construcción política para vaciar de contenido el autonomismo no pasaba cuando el tribunal constitucional denegó una ley parecida

aquí no aquí cuando se anuncia lo mismo

aquí es vaciar de contenido el autonomismo vasco en andalucía podía ser perfectamente simplemente defender los derechos fundamentales en este caso insisto la propiedad privada

en un problema de carácter político que solo tiene soluciones políticas cuando es un problema

y digo que sorprende que el partido socialista dé este espaldarazo a la estrategia del partido nacionalista vasco enhorabuena señor egibar enhorabuena han sumado ustedes al partido socialista a esta tesis

políticamente demencial y políticamente interesada una tesis que tergiversa la realidad y convierten ustedes insisto en algo excepcional con intencionalidad política aviesa algo que que el ejercicio ordinario de las administraciones en defensa de sus intereses pues bien qué han conseguido ustedes señores del partido socialista

en la que volvemos otra vez con el raca raca de siempre no pensamos en cómo ofrecemos un mejor servicio al ciudadano

sino como dice el partido nacionalista vasco y bildu ya se suma bildu también en su punto primero los incumplimientos en esta tesis

en términos sociales y económicos al conjunto de la ciudadanía vasca nada más y nada menos es decir una vez más el problema es de otros como hay un recurso a la ley de vivienda

no se ha presentado esto demuestra que todos los males que hay en euskadi son fruto de un enemigo exterior de un culpable exterior y no de quienes llevan gobernando salvo cuatro años ininterrumpidamente esta comunidad autónoma que alguna responsabilidad tendrán y cuando se habla en el segundo punto de que la voluntad política aprobada por este parlamento y tramitada en las cortes generales en el año dos mil cinco es decir el plan ibarretxe como demostración de la quintaesencia democrática no sabemos muy bien no estoy de acuerdo no sé a que viene más allá de una cuestión nostálgica señor egibar

en torno al estatuto se ha roto hace muchísimos años cuándo se rompió

a finales de los noventa ya estaba roto o se rompió después se rompió en ese momento

o cuando francisco álvarez cascos acudía cada dos por tres a sabin etxea ha sido invitado por ustedes para comer

esos son muchísimos años convendría saberlo o se rompe la lealtad

cuando el señor ibarretxe unilateralmente presenta el llamado plan ibarretxe

el gobierno central se tenían que haber callado el resto de formaciones políticas y haber tragado haber aceptado el trágala suyo con una parte de la izquierda abertzale se rompió ahí

al final de su última legislatura presentó el llamado plan ardanza también que rompía el consenso constitucional

la culpa siempre es de los demás va el partido socialista a seguir esta estrategia del partido nacionalista vasco

en los errores aciertos seguro que han tenido pero errores alguno también convendría que a la política vasca le pusiéramos algo más de sosiego y algo también de humildad muchas gracias

y sigo sin entenderle con ese argumento peregrino que ha

y de las nuevas políticas y del derecho a la consulta y del derecho a decidir porque estamos hablando en un punto concreto de defensa de dos leyes aprobadas por este parlamento pues según ese argumento supongo que usted cada vez que debatamos en este parlamento una proposición de ley un proyecto de ley o cualquier otro tipo de iniciativa legislativa que toque siquiera por asomo

de estas características porque es el mismo absurdo argumento que usted me ha empleado es decir si esto sirve para todo

correspondiente y además estos señores se lo compran últimamente cada vez más pues en fin creo que esto es hacer trampas en el solitario y no querer responder ante las propias responsabilidades que tiene

para no entrar en él hemos traído una iniciativa para garantizar el ejercicio de nuestras competencias

así de duro y así de simple las que tenemos reconocidas para que las defienda este gobierno

y por cierto señor sémper nosotros no hemos hecho aquí una referencia a que esto es una especie de conspiración antivasca

de pensar que a las autonomías y además lo han hecho explicito en artículos de opinión y en conferencias tienen que empezar a asumir más competencias en perjuicio de las autonomías del estado autonómico que tenemos en españa y que ha sido un modelo de éxito

nosotros y luego usted hace una interpretación como siempre parcial hoy a veces sí a veces no les llega las informaciones un tanto sesgadas señor egibar

toña hicieron declaraciones displicentes cuando se aprobaron las respectivas leyes pero es que es verdad

diciendo que la ley de vivienda iba a tener un efecto de llamada mundial nada menos planetario eso qué tipo de declaraciones eran

y que el lehendakari lo defendió por lo tanto cuando se dice una cosa se dice la otra salvo que se quiera inducir a engaño y nos estamos refiriendo en esta proposición a los ataques reales los que se concretan en este momento

por el gobierno de rajoy de impugnar dos leyes aprobadas por este parlamento claro usted

pero usted lo que me viene a decir es como se rompieron los consensos yo a cambio les propongo un disenso esa es la alternativa que ustedes nos proponen

yo apuesto por otra cosa qué es la otra cosa el disenso a sabiendas de que eso de entrada parte ya a la sociedad vasca por la mitad esa es su propuesta y yo les a ustedes señores del pnv y también a los señores del

señor sémper que dejen de dolerse de golpes que no han recibido y que no es seguro si quiera que se vayan a

sobre el cupo sobre el concierto sobre no sé qué postura de los socialistas

de algún dirigente destacado de su partido como el ex diputado general de álava el señor de andrés hace escasos días

son especialistas en sentirse agredidos en ponerse la venda con estrépito aunque no haya herida ninguna y de eso estamos asistiendo mucho a estos días porque el victimismo les ha ido bien pues es bueno seguirlo explotando no y ahora lo estamos viendo con el asunto del concierto y del cupo al que también ha hecho referencia sorprendentemente bildu no donde en lugar de hacer pedagogía optan por el melodrama es decir la vida es un puro teatro

del escenario más teatro que nadie y más postureo que nadie en lugar de explicar con razones en qué consiste la mecánica del cupo

tirar las patas por alto apropiarse del cupo como si fuera suyo de su propiedad

pues mire le voy a decir que no porque si alguna vez ha estado el concierto en el disparadero ha sido por culpa de ustedes cuando por un uso perverso y torticero de las vacaciones fiscales

con el concierto y fuimos los socialistas los que a través del abogado del estado porque el gobierno socialista había entonces los que conseguimos que la unión europea reconociese que en este país había

las cuatro de los territorios forales y la hacienda estatal y no ustedes ustedes lo que hicieron fue provocar que la unión europea llevase ese tema allí por mal uso del instrumento que se

y fue un gobierno socialista también el que propició que se modificase nada menos que la ley del tribunal constitucional y la del poder judicial para blindar las normas forales las de carácter fiscal que estaban también siendo objeto de cuestionamiento permanente por cierto por muchas de las autonomías

lecciones de defensa del concierto no se lo voy a admitir porque al concierto no se le defiende con declaraciones grandilocuentes sino con hechos

señor pastor yo cuando me he referido al concierto económico y a la discusión o el debate sobre el cupo

maniobras de distracción que de vez en cuando

cuando menos inducida se provocan debates entonces se provoca el debate sobre el concierto económico sobre la modulación o no del cupo etcétera en el que caen pues

necesitan opinar pues los que son responsables políticos o institucionales y esto tiene mucho que ver con lo que el portavoz del partido popular sémper me interpelaba

bueno el desarrollo del estatuto del autogobierno cuando gobernaba tal cual la calificación de uno o de otro cuando el incumplimiento del estatuto se convierte en algo estructural y el gobierno vasco o el partido nacionalista vasco con la representación en las cortes generales los diputados y senadores podía ser no determinante pero sí influyente es cuando se han producido los avances en el autogobierno y eso desde luego es la perversión de lo que puede ser pues una ley orgánica que es de obligado cumplimiento pero las necesidades políticas y parlamentarias de felipe gonzález del señor aznar y de los siguientes en la medida en que tuvieran necesidad y alguien podrá decir pues eso es mercadear pues será mercadear

todas las oportunidades para negociar y desarrollar el estatuto de gernika pero nadie se imagina

por lo menos en toda su extensión nadie se imagina que puedas tener un código de circulación

treinta y cinco preceptos están invalidados sería un caos circular porque no saben exactamente qué es lo que está vigente

se ha referido antes diez meses después de constituido el gobierno vasco después de haber refrendado el estatuto de autonomía hubo un golpe de estado y como consecuencia la loapa y la caracterización de esa loapa sí bueno sí dígame que lo desmonto el tribunal constitucional sí no el espíritu ha estado planeando

en la realidad política institucional del desarrollo de estatuto de gernika

se rompe cuándo se rompe desde que el mismo instante el año ochenta ochenta y uno cuando se empieza ya a incumplir el estatuto de autonomía y se somete todo a una renegociación es cuando empieza el incumplimiento del estatuto de gernika y solamente se ha desarrollado

es así no es nuestro punto de vista ni nuestra experiencia desde luego decía el señor maneiro hablando del derecho a decidir ha habido aquí dos intervenciones entre otras en la ponencia de autogobierno a una me refiero porque

tuvo responsabilidades aquí señor jáuregui y se le interpela y es literal

discutir sobre si una comunidad puede irse o cómo se alcanza la independencia etcétera pues es una cuestión que podremos discutir de muchas maneras pero que en mi opinión

para la separación sino una voluntad democrática de aceptar la negociación política con quien expresa esas mayorías ya veremos

o a la consulta previa a la negociación para la independencia porque realmente el estado no concibe que ese sea el destino lógico de su futuro

dice la constitución española no va a abrir las puertas al derecho a decir pero dice si de forma

transmitida en el tiempo se quiere alterar

y hay otra referencia periodística de este fin de semana muy interesante de otro ponente llamado por el partido socialista que habla de lo que son los procesos de legitimación social y habla de que el estado tiene que reaccionar y que tiene que ofrecer

legalidad inmutable se está produciendo un deterioro o una deslegitimación social de esa legalidad

a la que se tiene que presentar y de eso estamos hablando

y recoge la enmienda el segundo punto porque es un intento democrático plasmada en ley de este parlamento la de la modificación del estatuto de autonomía de gernika el vigente

este parlamento el treinta de diciembre del dos mil cuatro y se defendió

y no fue admitido ni siquiera a trámite para su discusión esa es la realidad y como esto va de unidades y de perfeccionar la unidad pues el partido socialista

caminando en esa carrera de perfeccionemos el proyecto de la unidad de españa

de ese estado unitario cerrado en sí mismo que no contempla otra realidad más que la propia nación española y ese no es el camino no es el camino que están proponiendo otros

decía no podemos no debemos jugar con el partido socialista de obrero español somos partido socialista obrero y español

hemos presumido ser el partido que vertebra españa el estado de las autonomías el código genético del psoe es vertebrar españa pues ábranse un poco al debate

derecho a decidir sí derecho a decidir no existe no existe

sí existe todas las constituciones democráticas modernas se basan en el derecho a decidir lo que digo que no existe es el derecho a decidir que ustedes plantean el derecho a decidir nacionalista que lo que finalmente propone es que

clave y la diferencia fundamental entre el derecho a decidir que yo defiendo y el derecho a decidir de los nacionalistas es decir para reformar la constitución deben decidir todos los ciudadanos españoles para reformar el estado debemos decidir

algo que el nacionalismo no asume por lo tanto cuando digo yo de falacia me refiero a la falacia del derecho a decidir de los nacionalistas que básicamente

los demás ciudadanos españoles que no puedan ejercer ese derecho a decidir en relación por lo tanto a la ley de vivienda ley del fracking sobre estas leyes ya nos posicionamos

nosotros en todo caso respetaremos lo que diga o lo que acuerde la comisión bilateral y lo que diga el tribunal constitucional efectivamente tanto el gobierno vasco como el gobierno de españa

inconstitucionales o vulneran determinadas competencias pero en todo caso unitario como el que tenemos porque tenemos un estado unitario y en un estado descentralizado porque tenemos un estado descentralizado es lógico y normal que pueda haber determinados conflictos competenciales que tienen que ser

en todo caso yo creo que lo que este debate evidencia son básicamente dos cosas que hay que reformar el estado autonómico y que hay que reformar la constitución

que el estado tiene que reaccionar efectivamente el estado tiene que reaccionar pero no para darles la razón a ustedes sino para quitársela para hacer de españa

más atractivo y mejor y más unido un país donde haya más igualdad y más bienestar no para que haya menos no para que se fraccione la ciudadanía sino para que sea efectivamente un país fuerte y unido dentro de una españa también fuerte y unida por lo tanto sí tiene que reaccionar y tiene que hacerse presente pero precisamente justo para lo contrario de lo que propone y por lo tanto habrá que reformar todo lo que sea reformable a través de los procedimientos legales establecidos y con la participación de todos los ciudadanos

autonómicos o convertirlo en cosa distinta de lo que es no para levantar nuevas fronteras interiores sino para acabar y derribar las que todavía existen y la segunda cosa que pone en evidencia este debate es la incoherencia del partido socialista obrero español no sé si con todas las letras o las letras que le queden y

lo que quiere el partido socialista obrero español no sabe lo que quiere y a mí especialmente

y también se evidencia no solamente la incoherencia del partido socialista obrero español que está en esa alocada carrera para tratar de ser un poco nacionalista

y el cupo y ahí está evidentemente también la incoherencia del partido popular por qué porque el partido socialista obrero español defiende

y porque el partido popular defiende una cosa en euskadi y cosa distinta en españa hace algunos meses en la propia asamblea de madrid el partido popular votó a favor de una iniciativa de upyd pidiendo la supresión del concierto económico y el cupo y estamos conociendo y estamos escuchando las declaraciones de diferentes dirigentes socialistas

de la cuestión las incoherencias y los complejos del partido popular y del partido socialista para defender la unidad de españa y para defender un país

y mejor donde efectivamente se defienda que haya más igualdad para el conjunto de los ciudadanos españoles porque los nacionalistas ya sabemos lo que quieren

que también el problema fundamental son los complejos y los miedos

y lo cierto y lo hemos escuchado en los últimos días es que el partido popular y el partido socialista en relación al concierto económico y el cupo defienden una cosa fuera de euskadi y dentro defienden otra y esto es así

comunidades autónomas y el pp dice cosas distintas en función de donde esté y el partido socialista dice cosas distintas en función de donde esté y evidentemente

quién se aprovecha de todo eso pues evidentemente los nacionalistas que están deseando que las debilidades del estado se agranden y puedan sacar tajada y seguir dando pasos hacia la independencia en todo caso en relación al concierto económico y al cupo

tendremos ocasión de debatir nuevamente a fondo en esta cámara porque
registrada ya una interpelación que después se convertirá en la correspondiente moción para que todos los grupos se retraten gracias eskerrik asko maneiro jauna

además de las acusaciones del señor pastor relacionada con rajoy que

al señor rajoy nos decía que nos sentíamos agredidos

es discrepancia política señor pastor su modelo federal

y su propuesta de reforma de lth lo desnaturaliza

aquí y en cualquier lugar el partido popular defiende el concierto económico aquí

antes ahora y seguro que mañana a diferencia de lo que hace

nosotros somos fiables y en ese sentido no tenemos ninguna duda

y cuando afirma que el incumplimiento estatutario es algo estructural

en el año ochenta y tantos como el inicio del incumplimiento estructural no sería tan estructural insisto cuando el señor arzalluz dice que aznar es un gran estadista

en trece años no sería tan estructural cuando en la legislatura pasada

y ustedes enredan para entorpecerlo no sería tan estructural cuando

y del estatuto en euskadi se han ido produciendo avances

no era coprotagonista o no participaba entonces había que enredar y entonces había que cuestionarse las transferencias como insisto la última la última gran transferencia en relación con las políticas activas de empleo y lo que sucede señor egibar es que vamos a ser claro

lo que sucede es que ahí se quebró la confianza y lo que no se puede hacer es pedir lealtad en el desarrollo estatutario cuando se está siendo desleal permanentemente cuando el partido nacionalista vasco por un lado enarbola el cumplimiento del estatuto de autonomía y por otro lado se desayuna y nos

con propuestas de ruptura del modelo estatutario porque

si mañana se cumplieran si mañana se ejecutaran las transferencias pendientes todas la semana que viene todas

seguiría abogando por la ruptura por el cambio de modelo estatutario por ese nuevo estatus político lo haría qué lealtad se puede esperar

pero por detrás dice que quiere romper ese mismo marco que ampara el desarrollo estatutario lo que tienen que hacer es un ejercicio de una vez de honestidad política señor egibar y en alguna ocasión se lo he dicho estos señores con los que discrepamos mucho

dicen que son independentistas y lo defienden ustedes no son tan claros y no son tan transparentes la pregunta es por qué la pregunta es por qué un día aparecen como adalides del desarrollo estatutario y otros días quieren un nuevo estatus político a qué le tienen miedo a la sociedad vasca

eso es u otra pregunta que nos deberíamos hacer también con absoluta transparencia qué hacemos en esa ponencia de autogobierno qué narices hacemos perdiendo el tiempo por lo visto en esa ponencia de autogobierno cuando ustedes ya adelantan lo que quieren que es el plan ibarretxe reeditado en el año dos mil quince dos mil dieciséis dos mil diecisiete cuando ustedes les convengan por supuesto no a la sociedad vasca

les convenga o el famoso derecho a decidir porque si ese es el final

porque en los discursos oficiales tanto el señor lehendakari como

en esta cámara la ponencia de autogobierno sirve y el lehendakari en muchas ocasiones ha respondido o no esto que lo decida la ponencia de autogobierno que acuerden que debatan

que es una medida excepcional para evadir el debate y para no decir lo que realmente piensan pero usted nos lo desvela también en sesiones parlamentarias y si algo tiene de positivo estos debates es que al menos conocemos otra posición del partido nacionalista vasco

y derecho a decidir aclárense pero no por ustedes sino por los demás para que podamos debatir en igualdad de condiciones con ustedes porque hurtar el debate y

hurtarnos a los demás de la posibilidad de debatir en igualdad de condiciones independentistas lo dicen y lo mantienen no independentistas lo décimos y lo mantenemos ustedes que son

aclárenoslo porque unos días quieren el desarrollo del estatuto de autonomía

ekimen bat gai honi buruz aurkeztea no es la primera vez que este grupo plantea esta iniciativa en esta cámara para que el gobierno vasco esperemos ya de una vez por todas financie la cobertura de las ayudas de emergencia social y así se cubra la demanda de las necesidades existentes

ha habido acuerdos algunos de ellos promovidos por este grupo parlamentario acuerdos concretamente el diez de octubre de dos mil trece el doce de junio de dos mil catorce el veintitrés de octubre

viendo que este gobierno incumple los mandatos parlamentarios y viendo que este gobierno no satisface de forma suficientemente las ayudas de emergencia social y la demanda existente

al gobierno vasco pues nos vemos en la necesidad nuevamente de presentar esta

sí que llama la atención que también el partido nacionalista vasco ha sufrido sus incoherencias en este debate concreto porque quiero recordar que uno de los primeros debates que precisamente planteó la portavoz de materia social

trae aquí el debate a la cámara una iniciativa sobre la que hubo un acuerdo por unanimidad

la totalidad de los estados de necesidad que se acreditaran que se acreditan en el concepto de ayudas de emergencia social y cuyos destinatarios cumplen los requisitos de la convocatoria

ese cambio de posición dos veces por parte del partido nacionalista vasco cuando ellos han gobernado nunca apoyan iniciativas de estas características

y luego cuando ellos otra vez toman las riendas del gobierno en la comunidad autónoma del país vasco

que se aprobaron que ellos impulsaron y votan que no también hay una incongruencia y creo que se va a manifestar hoy en esta cámara

la posición que va a mantener el grupo que apoya al gobierno el partido nacionalista vasco aquí con la que ha habido en el ayuntamiento de vitoria en los que todos los grupos por unanimidad

han alcanzado un acuerdo en el que se pide expresamente otra vez al gobierno vasco que

sufrague de forma suficiente estas ayudas de emergencia social

favorablemente a esa iniciativa porque ya digo que en el ayuntamiento se ha aprobado por unanimidad

que viendo sistemáticamente a parte de los incumplimientos y presentar las iniciativas también presentamos todos los años una enmienda a los presupuestos para que se

consignada para estas ayudas y también tengo que decir y aquí sí que tengo que meter al resto de los grupos no solo el grupo que apoye al gobierno sino que el resto de los grupos

dice que no pero obviamente no es baladí y también sobre todo viendo que los últimos acuerdos presupuestarios han ido de la mano estamos ante ayudas periódicas sí que es cierto que no son ayudas no hay un derecho subjetivo en relación a estas ayudas son ayudas recogidas en la ley para la garantía de ingresos y para la exclusión social la ley dieciocho barra dos mil ocho de veintitrés de diciembre como decía son prestaciones periódicas de naturaleza económica y subvencional destinadas a satisfacer

los recursos suficientes para hacer frente a gastos de carácter

necesario para estar o paliar situaciones de emergencia de marginación social

que se produce en un momento determinado y entonces es necesario cubrir estas situaciones económicas provocadas como decía por un acontecimiento

y se destinan al objeto para el que han sido concedidas como decía

porque siempre lo utiliza que no son ayudas configuradas como derecho subjetivo

ayudas configuradas como derecho subjetivo pero sí que hay previsiones contempladas en la ley para la garantía de ingresos y la exclusión social en la que

para garantiza todas las solicitudes es decir el gobierno vasco tiene una obligación

esas cantidades presupuestarias necesarias para satisfacer estas ayudas que luego se ven los ayuntamientos

competencia tengo que decir que también en relación a las ayudas de emergencia social este grupo ha planteado también iniciativas para que la orden anual de la concesión de las mencionadas cuantías anuales máximas a conceder

el gobierno vasco estaba siendo muy diligente y también ha habido un acuerdo en esta cuestión nosotros como decía planteamos una iniciativa

en esta cámara en relación a que se amplié la dotación presupuestaria para financiar las ayudas de emergencia social consignando en consecuencia la cantidad suficiente para garantizar todas las solicitudes que se reciban en los ayuntamientos durante

vigente y que regula esta cuestión también como siempre lo hemos hecho hemos instado al gobierno vasco a dar máxima prioridad a la tramitación de las

por parte de los ayuntamientos cada uno de los gastos específicos y también pedimos un esfuerzo nuevamente y anuncio que si no nosotros presentaremos como siempre la enmienda correspondiente

para atender todas las solicitudes de ayudas de emergencias social hemos llegado a un acuerdo de transacción tengo que decir que el acuerdo alcanzado reproduce

el acuerdo del ayuntamiento de vitoria gasteiz y a mí en principio me entró la duda de

apoyar el partido nacionalista vasco en esta cámara por una cuestión de coherencia política pues tendría que ser

apoyar lo que firma y lo que suscribe su representante político el señor urtaran a la sazón alcalde de vitoria gasteiz pero parece que no va a ser así

de que no se va a aprobar esta iniciativa salvo obviamente que nos sorprenda sí que digo que es la enmienda

de transacción acordada en el ayuntamiento de vitoria solo que

nos ha parecido oportuno en un primer punto hacer mención de que una vez por todas el gobierno vasco dé cumplimiento a los acuerdos aprobados en relación a la tramitación y financiación de las ayudas de emergencia social

la voz de esta cámara antes unánime cuando el partido nacionalista vasco estaba en la oposición y ahora no unánime es muy clara en relación a esta cuestión y por lo tanto hay un mandato parlamentario que ustedes deberían de cumplir y deberían ya de hacer caso del mismo más que nada para que

del gobierno vasco yo sí que quiero agradecer la voluntad de los partidos que han enmendado esta iniciativa el partido socialista eh bildu

en coherencia con la posición mantenida y que ha posibilitado una vez más que acordemos un acuerdo en el sentido que he descrito besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko garrido

egun on señorías quiero empezar mi intervención recordando que un total de ochenta ayuntamientos vascos tuvieron que aportar ocho coma uno millónes de euros en dos mil catorce

que nos dio el consejero toña aquí presente sobre la ejecución presupuestaria de estas ayudas en dos mil catorce

también quiero decir que hace casi un año se celebró en esta cámara el pleno

al paro y la pobreza y entre las resoluciones aprobadas ya se instaba al gobierno vasco a que teniendo en cuenta las especiales dificultades por las que pasan muchas familias numerosas y monoparentales para cubrir todas sus necesidades

que viven en situación de pobreza y exclusión social así como a quienes se están quedando sin ningún tipo de prestación por desempleo

hoy están excluidos arbitrando si fuera necesario las medidas para atender sus necesidades con las modificaciones reglamentarias

también se aprobó también se instaba a que

procediera a la modificación del decreto cuatro barra dos mil once incorporando un artículo a fin de garantizar la cobertura suficiente para responder a las necesidades económicas de las ayudas de emergencia social que se produzcan a futuro con carácter coyuntural y como consecuencia de situaciones de crisis económica como la actual

un estudio sobre la pobreza real derivada de la precariedad laboral y la insuficiencia salarial

de forma que se puedan adoptar a la mayor brevedad medidas directas que corrijan su situación y también a que se establezca una política integral de lucha contra la pobreza

a las diferentes manifestaciones y consecuencias sectoriales de la pobreza y a no considerar inmueble a los efectos de denegación de la prestación a aquellos inmuebles distintos de la vivienda habitual

total de ingresos y esto se aprobó en ese pleno

y en esta dirección trabajamos el grupo socialistas vascos durante toda la legislatura y quiero recordar cuáles han sido nuestras propuestas y nuestras iniciativas en octubre del dos mil trece debatíamos en esta cámara una pnl relativa a las ayudas de emergencia social

interpelábamos al consejero aburto sobre el cumplimiento de esa proposición no de ley aprobada en noviembre de ese mismo año el grupo socialista presentaba una pnl relativa

al gobierno vasco a que en un plazo de cuatro meses y en colaboración con las diputaciones y los ayuntamientos y en función de las competencias por supuesto que cada institución

para aquellos municipios y comarcas que por circunstancias especiales precisen de una acción coyuntural

favorecer la inserción socio laboral de las personas en situación de riesgo o exclusión social y el gobierno

en marzo de dos mil catorce preguntábamos al consejero de empleo y políticas sociales sobre el cumplimiento de este mandato precisamente relativo a ese plan especial contra

en octubre de dos mil catorce debatíamos nuevamente una pnl sobre la cobertura de las ayudas de emergencia social y una

al consejero sobre la ampliación de esa dotación presupuestaria destinada a financiar las ayudas de emergencia y en marzo del dos mil quince los socialistas presentamos una proposición no de ley para adecuar el decreto regulador de las ayudas de emergencia a las nuevas realidades que se están produciendo

a unas cuantas personas instábamos al gobierno vasco a que teniendo en cuenta tanto sus propios informes como los de las diferentes organizaciones sociales que ponen de manifiesto nuevas realidades y necesidades no cubiertas que conducen a padecer situaciones de pobreza y exclusión social dé los pasos necesarios para modificar a lo largo de este año dos mil quince

para atender gastos específicos que prevean o palien situaciones de exclusión social así como las nuevas situaciones de pobreza no cubiertas y que el gobierno presente en la comisión de empleo y políticas sociales y vivienda las modificaciones de dicho decreto antes de su aprobación

pero parece que este gobierno hace oídos sordos no solo a los acuerdos de este parlamento también a las peticiones de los ayuntamientos vascos

y a los de las organizaciones sociales que ponen de manifiesto nuevas realidades y necesidades no cubiertas que conducen a padecer situaciones de pobreza y exclusión social hoy debatimos de nuevo una proposición no de ley sobre la financiación de las ayudas de emergencia social

en los mandatos de este parlamento y apela al gobierno para que no haga oídos sordos a las demandas sociales de aquellas personas que peor lo están pasando

a sus propiosinformes y también a los informes de las organizaciones sociales estamos a la espera de que el gobierno vasco proceda a la modificación del decreto tal y como se recoge en el mandato parlamentario del cinco de marzo mientras tanto

proceda a ampliar la dotación presupuestaria destinada a financiar las ayudas de emergencia social

una cantidad suficiente para poder garantizar la satisfacción de las ayudas que están recibiendo los ayuntamientos durante este año dos mil quince y que cumple con los requisitos recogidos en la ley y en la propia orden

y a que dé máxima prioridad por supuesto a la tramitación de esas oportunas

de recursos en definitiva instamos al gobierno vasco a que cumpla con los acuerdos de este parlamento y termino diciendo que efectivamente el treinta y uno de julio

una moción que recogía precisamente los acuerdos que tenemos en este parlamento y que hoy también recogemos en la enmienda de transacción

espero y deseo que también tenga el mismo apoyo unánime que ha tenido en ese ayuntamiento de gasteiz

alcalde del ayuntamiento es del partido nacionalista vasco por mi parte nada más